este es el momento de la transparencia y la rendición de cuentas de responder a los compromisos asumidos ante la ciudadanía y este parlamento rendimos cuentas en tiempo real

recibió cincuenta y seis millónes de visitas el pasado año con doscientos veintitrés millónes de páginas vistas hemos hecho públicas las

euskadi ha alcanzado cien puntos sobre cien en el índice de transparencia internacional

los ciento setenta y cinco compromisos de nuestro programa están en marcha

hemos aprobado quince proyectos de ley y cinco proposiciones de ley han sido presentadas por los partidos que sustentan al gobierno de los veinte proyectos remitidos a la cámara

el resto once proyectos se encuentran en tramitación desde dos mil diecisiete los de transparencia participación ciudadana y buen gobierno

desde dos mil dieciocho cooperativas garantía de ingresos y para la inclusión social y potestad sancionadora de las administraciones públicas este año los proyectos de ley de empleo público vasco centros de culto

y administración ambiental mantenemos nuestro compromiso de remitir a esta cámara veintiocho proyectos de ley estamos trabajando

como aportaciones régimen de subvenciones modificación de la ley para la igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres modificación de la ley de desarrollo rural protección de la infancia y la adolescencia movilidad sostenible educación

gestión documental integral cambio climático o juventud paso a paso vamos avanzando y sinceramente pienso que el rumbo es correcto

bide onean goaz somos un país solvente hemos asentado la consolidación fiscal con una gestión rigurosa de las cuentas públicas este es un activo que ofrece confianza a la inversión euskadi es nuestra garantía y estamos haciendo lo necesario para que lo siga siendo

la base de nuestra estrategia económica es firme contamos con una estrategia compartida el programa marco por el empleo y la reactivación económica dos mil veinte nos está permitiendo movilizar una inversión de ocho mil ochocientos millónes de euros

hemos incrementado los recursos destinados a garantizar los servicios esenciales de salud educación y protección social nuestra prioridad es social

año a año se han incrementado este ejercicio destinamos

el gasto social suponía el sesenta y dos por ciento del presupuesto en dos mil trece

el gasto en protección social por habitante se sitúa cinco puntos por encima de la media europea el índice gini indicador de desigualdad

la tasa de pobreza grave en euskadi se mantiene en el cinco coma uno por ciento por debajo del seis por ciento de la media europea

somos muy conscientes del nivel de incertidumbre en el que se encuentra nuestro entorno

y valorar las tendencias sociales se hace más necesario para asentar la estrategia europa y el mundo afrontan importantes tensiones

el brexit mantiene en la incertidumbre la visión de futuro de europa la economía alemana puede cerrar este trimestre en negativo y encontrarse en recesión es un mercado importante para euskadi en el ámbito industrial y de la automoción

subrayó ayer los escenarios de gobernabilidad

esta situación tiene un especial reflejo en el estado las tensiones económicas sociales y territoriales son crecientes la repetición electoral supone

los retos que mantienen atenazada la acción política e institucional en el estado vivimos tiempos de gran incertidumbre provocada en ocasiones

incertidumbre acentuada por el desconocimiento de las consecuencias de una posible crisis económica si a esto se suma la ligereza con que se aborda la acción política tomando sin demasiado fundamento y rigor decisiones claves que afectan al futuro

euskadi es un país pequeño y no nos vamos a sustraer a las consecuencias de las actuaciones y tensiones que determinadas políticas populistas están provocando son actuaciones agravadas por la facilidad con la que consignas simples

se propagan a la velocidad del rayo todo ello afecta a la estabilidad en el estado y puede afectarnos en euskadi aquí sabemos que

tenemos más posibilidades de que el coste social sea menor aprecio la importancia del compromiso y el trabajo diario la hormiga que atesora en verano lo que necesitará en invierno déficit cero

no podemos hacer nada para evitar una crisis global sí podemos tratar de mitigar sus efectos debemos anticipar soluciones y ejecutarlas en un marco de colaboración somos un país solvente

con visión estratégica compartida e inversiones que mantienen nuestra competitividad hemos asentado la consolidación fiscal con una gestión rigurosa este es un activo que ofrece confianza a la inversión y aumenta el atractivo del ecosistema económico vasco

la estabilidad es nuestro mejor activo político para el crecimiento entiendo la política como vocación de servicio a la sociedad y como instrumento para resolver los problemas de la ciudadanía

debemos tener presente que lo importante es dar respuesta a las necesidades de las personas especialmente las más necesitadas debemos actuar desde la seriedad y la responsabilidad

y buscar un reparto más justo y equitativo de la riqueza una política de servicio me preocupa y mucho la situación política en el estado es descorazonador lo que está ocurriendo nuevo llamamiento a elecciones generales con incapacidad de trazar cualquier vía de acuerdo y sumida en estrategias partidarias sin compromiso institucional y sin proyecto compartido a medio plazo no es menos preocupante lo que sucede en europa reitero el ofrecimiento de la visión sobre el futuro de europa presentada a los máximos representantes institucionales europeos

el mundo está en hilvanes me gustaría poder afirmar ante la sociedad vasca que no vamos a tener que afrontar incertidumbres no puedo hacerlo

sí puedo afirmar que la estabilidad con que contamos en euskadi es fundamental tenemos una economía saneada

somos una sociedad equilibrada que garantiza los servicios esenciales y la protección social nuestra previsión es que vamos a seguir creciendo algo menos

en el contexto actual no podemos dar por segura esa tendencia sí podemos dar por hecho nuestro empeño en garantizar las condiciones para que esa tendencia se mantenga en euskadi

nuestro empeño es crear más y mejor empleo poner el autogobierno al servicio de la modernización

nuestro empeño es preservar la estabilidad política e institucional es lo que estamos haciendo visión seriedad y compromiso

plan director dos mil veinte que materializa el derecho subjetivo a la vivienda proyectos de regeneración integral en txomin enea txonta zorrozaurre sestao otxarkoaga y basaundi en lasarte

rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia energética y accesibilidad

somos una comunidad pionera en el compromiso con la igualdad aun así somos conscientes del camino que nos queda por recorrer el objetivo es

cada acto de violencia es una llamada de atención a toda la sociedad

el gobierno asume la responsabilidad de seguir trabajando por la igualdad para evitar de raíz

intolerable este año aprobaremos la modificación de la actual ley para la igualdad que incorpora un capítulo específico para erradicar esta violencia que reforzaremos necesitamos seguir trabajando en equipo auzolana

recoge sesenta medidas y compromete un presupuesto de doscientos ochenta millónes de euros estos dos años algunas iniciativas

permisos de parentalidad de dieciocho semanas de forma paritaria y no transferible en la administración pública ayudas a empresas para realizar planes de igualdad

grupo de trabajo en la mesa de diálogo social para reducir la brecha salarial euskadi mantiene el objetivo de situarse entre los países europeos más avanzados en igualdad

familia infancia y juventud en dos mil dieciocho aprobamos el pacto interinstitucional

incremento de un treinta y tres por ciento en dos años de las ayudas a las familias por hijos e hijas extensión de la ayuda por nacimiento del segundo hijo hasta los tres años

solidaridad con las personas mayores y las más desfavorecidas estrategia del tercer sector social y acuerdo interinstitucional para personas sin hogar

un mínimo vital en aquellos casos de riesgo de vulnerabilidad dotación de catorce millónes anuales adicionales al fondo para el desarrollo de la cartera de servicios sociales

actuaciones en trabajo justicia y seguridad decreto de asistencia jurídica gratuita plan de inspección del departamento de trabajo para evitar el fraude en la contratación primer decreto para la institucionalización de la mesa de diálogo social ley de policía de euskadi

gestión de tres convocatorias unificadas para la formación de setecientos policías locales nuevo espacio de hemen gaude en el museo de arkaute en memoria de las y los ertzainas asesinados por eta

crecimiento sostenible primero el empleo el reto prioritario de la legislatura es reducir la tasa de paro por debajo del diez por ciento para dos mil veinte es este momento se sitúa en el nueve coma seis por ciento hace tres años había ciento cuarenta y cuatro mil personas registradas en lanbide

contábamos con novecientos cuatro mil personas afiliadas a la seguridad social

hemos dado un impulso al emprendimiento formación para el empleo transición del mundo educativo al laboral y formación dual

hemos desarrollado los planes locales y comarcales de empleo centros especiales de empleo y programas renove

estamos procediendo paulatinamente al relevo generacional de la administración y a consolidar los servicios públicos de salud educación seguridad o protección social

industria innovación inversión e internacionalización industria e innovación plan basque industry cuatro punto cero que compromete

nuevas infraestructuras centro vasco de ciberseguridad ampliación del parque tecnológico de la margen izquierda centro de fabricación avanzada aeronáutica

nuevas instalaciones del centro de investigación achucarro biocruces y bioaraba banda ancha en todos los polígonos industriales y zonas rurales de euskadi programas de apoyo a la reactivación plan de choque para zonas de actuación preferente plan renove vehículos maquinaria y polígonos industriales reactivación económica del sector terciario plan estratégico de turismo comercio y consumo

decreto regulador de viviendas y habitaciones de uso turístico impulso a la internacionalización del turismo y programas del departamento para un turismo sostenible y de calidad

crecimiento anual superior al cinco por ciento de los presupuestos públicos hemos agrupado los dieciséis centros tecnológicos y de investigación cooperativa

estrategia marco aprobada en colaboración con diputaciones forales cámaras de comercio y empresas agencia vasca de internacionalización y nuevas oficinas de spri en milán londres y nueva york los resultados son positivos

novecientos pequeñas y medianas empresas han recibido apoyo para su expansión en el exterior las exportaciones y la llegada de visitantes siguen creciendo el instituto etxepare despliega su labor cultural y la cooperación vasca para el desarrollo es un referente internacional inversión la inversión pública crece este ejercicio

ha sido posible gracias a la consolidación presupuestaria del ejercicio pasado y la confección de un programa de inversiones sostenibles que no computa en la regla de gasto nos permite abordar proyectos de modernización de nuestras infraestructuras centros

desarrollo de la red de metro y tranvía red de alta velocidad y acuerdo con el gobierno español para el acceso a las capitales

incluyendo el desarrollo rural con actuaciones también en los municipios más pequeños nuestro objetivo es garantizar el desarrollo de todo el territorio a la misma velocidad

crecimiento y arraigo de las empresas inversiones de hasta seis millónes de euros desde los fondos gestionados por capital riesgo del país vasco fondo público privado para consolidar proyectos empresariales abierto con cien millónes de euros y ampliable hasta doscientos cincuenta

el objetivo es contribuir al arraigo y que estas empresas ejerzan su carácter

sobre el tejido productivo contamos con un compromiso de cien millónes de euros para la presente legislatura talento y emprendimiento

ikerbasque ha reforzado su papel de captación y retención de talento

con una captación de veintiocho millónes de euros el ejercicio anterior medio ambiente y sostenibilidad estrategia ambiental de desarrollo sostenible dos mil dos dos mil veinte y klima dos mil cincuenta

el treinta de julio el consejo de gobierno aprobó una declaración institucional de emergencia climática reafirmando la convicción de liderar este desafío y convertirlo en palanca de transformación hacia una economías más competitiva y climáticamente

del estado redacción del plan de renovables que plantea un mapa para las distintas modalidades incluida la energía eólica mejora de la movilidad sostenible plan director del transporte sostenible dos mil treinta programa ibil de electrolineras en euskadi bus eléctrico inteligente en gasteiz y donostia

reducido un veintiuno por ciento la emisión de gases de efecto invernadero con respecto a dos mil cinco nuestro índice de eficiencia energética se encuentra entre los más elevados de europa

reitero el espíritu mano tendida para unir fuerzas al servicio de euskadi he realizado un balance un somero balance del camino recorrido valorar lo realizado es compatible con una actitud de máxima autoexigencia con la tarea pendiente nada de autocomplacencia

es el criterio de actuación de nuestro gobierno esta actitud es más necesaria que nunca porque somos conscientes de las dificultades que atraviesa la sociedad

me refiero a los niveles salariales la temporalidad o el empleo a tiempo parcial las dificultades de empresas y sectores de actividad que seguimos muy de cerca

especialmente a las personas mayores y agudizan problemas como la soledad las dificultades de integración social y laboral de las personas migrantes la emisión de gases de efecto invernadero las dificultades para invertir en innovación de muchas pequeñas y medianas empresas

revertir los bajos índices de natalidad la brecha territorial en comarcas que han sufrido con más crudeza la crisis económica

son problemas que conocemos de cerca van a seguir centrando nuestra atención hemos avanzado pero nos queda mucho camino por recorrer autoexigencia nuestro empeño obligado y sentido

adelanto hoy algunas de las iniciativas que el gobierno va a impulsar estos próximos meses bigarren atala beraz garatu beharreko ekimen nagusiak

plan integral para los juzgados de violencia contra la mujer nuevo punto de encuentro familiar en irún estrategia de apoyo a personas cuidadoras no profesionales digitalización del veinticinco por ciento del servicio de teleasistencia de betion

que regula los permisos de paternidad de dieciséis semanas en el sector privado pacto social vasco para la migración el objetivo es impulsar un compromiso de país ante el reto migratorio un pacto que define proyectos en materia de inmigración regularizada

migrantes en situación de vulnerabilidad o en situación no regularizada menores y jóvenes extranjeros no acompañados intervención preventiva y cultura de convivencia

y ha sido acogido ahora debemos ser un país acogedor por solidaridad por derechos humanos y también por necesidad

este pacto conlleva asumir un compromiso de corresponsabilidad firmeza y unidad

crecimiento sostenible reducir el paro por debajo del diez por ciento es un acicate para lograr más empleo y de mayor calidad es la prioridad del gobierno y del país el reto es mejorar nuestro ecosistema y construir un nuevo futuro económico apoyar a la empresa ganar competitividad en la industria abrirnos paso en el mercado global

nuevo modelo de lanbide en colaboración con los diferentes agentes infraestructuras de comunicación tren de alta velocidad y acceso soterrado a las capitales

plataforma multimodal de júndiz e impulso a la autopista ferroviaria infraestructuras para la competitividad

de materiales en el campus científico de leioa digitalización de lanbide y nuevas oficinas en vitoria gasteiz programa de atracción de talento tecnológico industrial polígonos acuícolas de mendexa y basordas

tercero convivencia y derechos humanos alcanzar una reflexión crítica global sobre el pasado que

ampliar los espacios constructivos y participativos de consenso en materia de memoria así como de reconocimiento

de las víctimas alcanzar un consenso sobre política penitenciaria y reinserción adaptado al nuevo tiempo político y ajustado al principio humanitario ley de memoria histórica tras un proceso de evaluación de lo realizado hasta la fecha hemos elaborado un borrador que compartiremos con los grupos parlamentarios

proyecto piloto de naciones unidas para la prevención de la radicalización violenta línea de trabajo compartido para ampliar la cooperación para el desarrollo

la acogida integración de personas refugiadas y migrantes la migración

es una realidad estructural que requiere una concertación europea están en juego los valores e ideas fundacionales o ideales fundacionales del proyecto europeo europa tiene la necesidad objetiva de la aportación de las personas inmigrantes la respuesta al reto migratorio es un imperativo de solidaridad un imperativo de progreso

de la responsabilidad sea compartida tras el apoyo recibido en el vaticano vamos a seguir promoviendo esta propuesta en euskadi

el gobierno español las instituciones europeas e internacionales el espíritu de esta propuesta es pedimos y ofrecemos un compromiso

ofrece un modelo histórico singular legítimo legal bilateral y eficaz para su extensión al ámbito de la relación política concierto político

acuerdo de concertación nacional en euskadi y pacto de garantía bilateral con el estado un nuevo futuro político basado en la confianza recíproca que permita ampliar la potencialidad del autogobierno con un mecanismo de resolución de conflictos asentado en la bilateralidad

tenemos la oportunidad afianzar el autogobierno y avanzar en su singularidad

reforzar la construcción institucional de euskadi y asentar el espíritu originario de pacto y bilateralidad con garantías

la oportunidad de impulsar un nuevo modelo de estado que reconozca su realidad plurinacional

de participar en la construcción de una europa de una nueva europa que reconozca la singularidad de sus propias regiones constitucionales y realidades nacionales

en el marco de la ponencia de autogobierno la comisión de las personas expertas designadas por los cinco grupos parlamentarios

han desarrollado su trabajo con plena dedicación y entrega aportando su mejor conocimiento y experiencia al servicio de un objetivo de primer nivel para nuestro país

loable la actitud constructiva la ilusión compartida el treinta de noviembre presentarán el fruto de su trabajo la actualización del autogobierno merece el esfuerzo de los cinco grupos parlamentarios

este proceso es un ejemplo de cultura política un contrapunto a la realidad que vivimos en el estado actitud proactiva frente a la pura inercia que trata de limitar la potencialidad del autogobierno vasco asunción de la realidad plural

en la génesis y desarrollo del conflicto territorial entre cataluña y el estado orientación al pacto frente a las actitudes de bloqueo veto

actitud proactiva pluralidad diálogo multilateral pacto definen una visión y un modelo de hacer política que nos corresponde alentar en euskadi representan la esencia de nuestro compromiso político e institucional ante la sociedad tanto por el contenido como por la forma en que desarrolla su labor expreso mi más sincero reconocimiento al trabajo de las personas integrantes del llamado grupo de expertos

el deseo de que este trabajo permita ensanchar

y ampliar el acuerdo interno para avanzar en nuestro autogobierno creo en la capacidad de un autogobierno dinámico para afrontar

esta capacidad debe aplicarse en el día a día de la relación institucional es imprescindible una interlocución con plenas funciones por parte del gobierno español un objetivo fundamental de nuestro gobierno es la defensa de lo que corresponde a euskadi y nos permita progresar la agenda vasca

esta agenda incluye materializar las trasferencias pendientes impulsar las inversiones para avanzar en la alta velocidad

apoyar la industria y la trasformación energética garantizar el futuro del sector de la automoción

la agenda vasca comprende cuestiones relevantes para el día a día de euskadi y nuestro futuro son cuestiones que no pueden seguir aparcadas por la inestabilidad en el estado por el clima electoral permanente o la ausencia de una interlocución en el gobierno español el nuevo escenario electoral de nuevo la puesta en marcha efectiva del gobierno español no facilita el clima de confianza y trabajo que exige la respuesta a las necesidades de la agenda vasca

aunando fuerzas apostando por la colaboración la concertación público privada y la participación de la sociedad euskadi es nuestro bien común

este objetivo de mejora tiene su reflejo en el anteproyecto de presupuestos dos mil veinte que aprobaremos el próximo mes una propuesta elaborada por primera vez desde el enfoque de la igualdad de mujeres y hombres

somos conscientes de la necesidad de lograr la facilitación de los grupos de esta cámara adelanto hoy diez prioridades que va a contemplar

programas de innovación especialmente relacionados con la transición energética y el cambio climático zonas de actuación preferente para su reactivación económica y social apoyo al empleo juvenil de calidad a las personas desempleadas de larga duración y refuerzo de los planes de inspección laboral para eliminar el fraude

planes específicos contra la brecha salarial y prevención de la violencia contra las mujeres acceso de la mujer a la industria y a los estudios de ciencia y tecnología

mejora de la atención primaria sanitaria fondos de apoyo al tejido productivo competitividad atracción de talento y arraigo de las empresas vascas

este es el marco de prioridades para un presupuesto dos mil veinte que va a primar la igualdad cohesión social reactivación económica

termino este apartado con una mirada al horizonte dos mil treinta el rumbo de euskadi esta trazado va a ser necesario responder con eficacia a la triple transformación en el escenario global demográfico social energético ecológica

esta transformación tiene un signo global y se está produciendo por el descenso de la natalidad el retraso en la edad de maternidad

el declive demográfico constituye en europa un problema declarado y de primera magnitud en euskadi

la segunda tasa más baja de la unión europea la importancia de este tema para el futuro de euskadi

nuestro programa explicita la previsión de promover una estrategia interinstitucional para el cambio demográfico y el rejuvenecimiento de la sociedad vasca

este fue uno de los cuatro retos de país planteados en el debate de investidura

en materia de permisos parentales hemos adoptado una posición pionera y de convergencia con las políticas más avanzadas de la unión europea hemos avanzado paso a paso ahora debemos

elaborar la estrategia dos mil treinta en materia demográfica que además de las iniciativas en marcha incorpore una batería de nuevas actuaciones tractoras a tal efecto se creará un grupo de trabajo interdepartamental

avanzar en la implantación de medidas que promuevan la corresponsabilidad en las tareas de cuidado aumentar progresivamente la inversión en las familias

mejorar las ayudas a la natalidad mediante prestaciones económicas y ventajas fiscales plan de vivienda especialmente pensado para jóvenes

avanzando en la escolarización temprana entre cero y dos años socialización de la aportación de la migración y la necesidad de medios en materia de permisos de residencia trabajo cualificación profesional y apoyo a la integración plan de concienciación social para poner en valor la corresponsabilidad

el compromiso con las generaciones futuras el cambio demográfico rompe a medio plazo los equilibrios básicos de un proyecto de sociedad cohesionada

y alcance estratégico políticas de apoyo a las familias y la natalidad ayudas a la conciliación inversión en educación infantil

pasarán a tener una clara prioridad en la agenda presupuestaria de la próxima década segundo transformación energético

la sociedad es cada vez más consciente de la degradación ambiental originada a modo de consecuencia no deseada por las actividades encaminadas a garantizar nuestro desarrollo y bienestar frente a esta realidad podemos reaccionar con diferentes actitudes

alarmar o emprender hemos adoptado la actitud de emprender acciones enfrentar los problemas con la convicción de que son una oportunidad

a la vez que un imperativo social y político el debate no es ecología versus economía la meta es el desarrollo sostenible

de enorme magnitud la reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero es un objetivo de país mantenemos

este compromiso va a implicar la consecución de objetivos intermedios en dos mil veinticinco y dos mil treinta

el cambio de modelo productivo y la transición energética plantea una gran oportunidad para la actividad económica y el empleo primaremos actuaciones concretas generación de electricidad con fuentes renovables impulso de la movilidad eléctrica y electrificación del sector transporte rehabilitación de edificios

responsable y sostenible mejora en la eficiencia energética de los procesos productivos en la industria reparación y reutilización de materiales o maquinaria

fomento de la bioeconomía forestal a partir de recursos biológicos renovables especialmente los forestales transformación de la actividad agraria

sensibilización y conciencia social en favor del medio ambiente

hiri jasangarriak klima aldaketa kultura eta sormen industriak esta transformación implica un proceso de adaptación y transición de nuestras empresas

necesitamos que las empresas busquen alianzas crezcan en tamaño y dimensión afronten los retos de competitividad e internacionalización desde la cooperación

empresas con una nueva forma de entender las relaciones entre las personas que la integran empresas más inclusivas y participativas arraigadas en nuestro país y que respondan mejor

favorecer la participación y propiedad en una empresa entendida como proyecto común es también una inversión en competitividad nuestra determinación es alentar este nuevo modelo de empresa inclusiva y participativa que cuenta con el respaldo unánime de todos los grupos de esta cámara

la triple transformación demográfico social energético ecológica y tecnológico digital es una oportunidad

contamos con un marco definido por la agenda dos mil treinta y los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible con un rumbo concretado en el programa de gobierno contamos con un modelo institucional y social de colaboración defendemos la misión de seguir construyendo juntos

el rumbo es correcto y con la máxima autoexigencia vamos a seguir avanzando paso a paso avanzar gracias a los acuerdos políticos e institucionales

acuerdos que fortalezcan una estabilidad que se está demostrando positiva al servicio del crecimiento económico y la generación de oportunidades de empleo de mayor calidad

preservar la estabilidad política y la acción de gobierno somos conscientes de la composición de este parlamento

no someteré a euskadi a la tensión política que estamos conociendo en españa

aquí se ha mantenido el diálogo político entre los partidos que sustentan al gobierno a quienes agradezco su respaldo y confianza

se ha unido para dar cumplimiento a su programa actuando con la máxima lealtad también se ha preservado el diálogo con los tres grupos de la oposición

de todo lo que se dice aquí se han alcanzado acuerdos cito tan solo a modo de ejemplo la ley de instituciones locales o municipal

para garantizar el cumplimiento de todos los compromisos acuerdos con eh bildu con elkarrekin podemos con el partido popular

la mano del gobierno vasco sigue tendida se han alcanzado acuerdos

se ha avanzado en la ejecución del programa de gobierno esta es la prioridad estabilidad política para el país y la acción de las instituciones diálogo con voluntad de acuerdo haré todo lo que esté en mi mano para mantener en euskadi el compromiso y la responsabilidad con una política útil

contamos con las iniciativas que necesita euskadi para afrontar el futuro vamos a seguir ejecutando la agenda de gobierno una agenda basada

garantizar los servicios públicos esenciales para la calidad de vida y el equilibrio social primar las inversiones de modernización y desarrollo futuro de euskadi avanzar en convivencia y justicia social actualizar el potencial del autogobierno vasco sobre esta base de estabilidad gobernabilidad y futuro estamos preparados para afrontar las grandes transformaciones de nuestro tiempo

un país competitivo capaz de generar riqueza y empleo en un escenario más abierto y global un país integrado capaz de garantizar el desarrollo de todas las personas

articulado territorialmente y abierto capaz de construir y decidir su propio futuro

euskadi es un país con raíces sólidas y ambición para seguir creciendo paso a paso conseguirlo es posible desde la esencia de la política diálogo

y colaboración creo en la política ejercida con visión seriedad y compromiso tenemos un modelo y una forma de hacer política